y con esta simple verdad del barquero no solo catalizan el malestar con la inacción política y empiezan a señalar responsables sino que desvelan estaba desnudo resulta que nuestro desarrollo en contra de toda la propaganda oficial no era sostenible porque el desarrollo sostenible estaba basado en una sola idea

de las generaciones siguientes era un pacto intergeneracional un pacto roto y era obvio llevábamos

estábamos funcionando por encima de la capacidad de carga del planeta estábamos consumiendo recursos a crédito

acumulando muchos de ellos en la atmósfera y claro es como orinar hacia arriba y ahora nos llueven los problemas agotamiento de recursos claves

emergencia climática nos han pillado los jóvenes y reclaman que digamos la verdad y les tenemos que explicar que nos hemos consumido una parte de lo que les tocaba

que llevamos décadas hablando de la reducción del consumo y consumiendo cada año más con un sistema incapaz de distribuir riqueza

a los límites del planeta con nuestro desarrollo sostenible no sostenible eta orain larrialdia larrialdietan urte luzez aritu garenok

lehendakariorde sailburu legebiltzarkide guztioi egun on el pasado treinta de julio

en la declaración se decía textualmente que se

acciones urgentes y ambiciosas en el conjunto de las políticas desarrolladas por el gobierno el próximo lunes será treinta de octubre habrán pasado tres meses

el otro día en la comisión de medio ambiente definimos esta emergencia como la emergencia tranquila hay emergencia pero nosotros nosotras a nuestro paso

entre la juventud vasca donde hay intranquilidad es entre la comunidad científica que están quedándose de advertir que se acaba el tiempo la emergencia tranquila que tenemos aquí en euskadi la emergencia climática tranquila se tiene que convertir de menos palabras a más hechos de menos declaraciones a más acciones y eso es en última instancia lo que vamos a debatir hoy gaur

de hoy como digo no es tanto si tenemos que declarar la emergencia climática o

el señor otero efectivamente estamos demostrando con esta declaración que nuestro sistema económico social y político a día de hoy es insostenible para el planeta lo que está en debate en este punto del orden del día hoy son los plazos y los tiempos con los que tendremos que actuar

real si la estamos considerando como una emergencia tranquila el debate es cuándo tiempo tenemos y cuánto tiempo necesitamos para adoptar las medidas

es que tiempo es precisamente lo que no nos sobra es cierto

y lo defenderá que son necesarios acuerdos amplios que son necesarios consensos que es necesario

económica y el empleo y eso son consideraciones que nuestro grupo comparte lo que no compartimos es la tesis que por ejemplo

de decir textualmente que sería suicida poner en riesgo nuestra actividad económica esos mensajes confunden

y esos mensajes llevan a la inactividad porque en ese tema hay dos tentaciones una tentación es la de no actuar

mencionar la tentación de no actuar pues bien la unión europea ha dicho que el coste de no actuar es de doscientos cuarenta mil millónes de euros en la unión europea

lo tenemos ya todos los días en las páginas de los periódicos

del mes de junio el cambio climático amenaza con plagas y alteraciones de la uva en rioja alavesa periódico

del gobierno revela que el cambio climático obligara a varias especies de atunes entre ellas el bonito

obligando a los arrantzales a viajar más para poder capturarlos

ese es el coste de no actuar y este coste de no actuar lo tenemos ya hoy

el colectivo que está protestando fuera el de trabajadores y trabajadoras del sector vinícola alavés son en última instancia quienes van a pagar las consecuencias de no actuar

la uva de rioja alavesa empiece a ser menos rentable

quienes van a perder van a ser los empleados y empleadas que trabajan en ese sector por lo tanto tengo una mala noticia no actuar no es una opción

esperar a que alguien dé el primer paso y ser nosotros o nosotras los segundos o los terceros o los décimos para ver si no nos equivocamos lo que yo llame en un debate la conducta retrasista tampoco es una opción

porque los ahorros de actuar contra el cambio climático multiplican por dos coma cinco los costes que este nos va a suponer y porque actuar ahora ser los primeros ser pioneros pioneras en la lucha contra el cambio climático nos permitiría poner en marcha una economía sostenible

y resiliente y nos permitirían crear algunos de los sesenta y cinco millónes de puestos de trabajo que

que se iban a crear en el mundo en la lucha contra este reto global

decía en esa conferencia decía es necesario acelerar el cambio del cambio

porque la respuesta es un sí la pregunta tampoco es de qué forma porque están los recursos y la tecnología para ello la cuestión radica en el cómo lo podemos acelerar

está de acuerdo en que en esa aceleración es necesario el acuerdo y el consenso pero lo que no puede suceder de ninguna manera es que llegue la parálisis

climáticas y esas son las que nos faltan en nuestro país orain arte herri honetan egin diren politikak

eta haiek botatzen dituztelako mezu zuzenak kontu honetan la importancia de los mensajes correctos me he referido anteriormente el consejero arriola habló de que sería suicida cambiar

actividad económica yo diría hoy aquí que lo que es suicida es seguir quemando el sesenta por ciento de nuestros residuos lo que es suicida

lo que es suicida es gastar doscientos millónes de euros en cuatro kilómetros de autovías y lo que es suicida es que dos de cada tres desplazamientos en euskadi motorizados se hagan en un vehículo privado ocupado por uno coma dos personas

va a seguir actuando como siempre ajena a las tendencias globales existentes hoy en día y por eso los y las jóvenes en la calle nos dan dos mensajes correctos uno que no hay que actuar por razones económicas sino por obligación

no tenemos derecho no tenemos derecho a cambiar el clima ni tenemos derecho a cambiar una especie por eso ellos y ellas gritan ni un grado más ni una especie menos el futuro no nos pertenece el futuro es de la juventud que está en las calles y por eso nos gritan que les estamos robando el futuro

afrontó otros retos afrontó otros retos medioambientales y otros retos sociales en euskadi y fuera

a nosotros y nosotras a los que ya tenemos una edad nos tocó en su momento luchar por nuestro futuro hoy en día nos toca les toca luchar por su futuro pero

porque como dijo susan george otro mundo es posible pero hay que pelearlo y en eso estamos hoy aquí en el parlamento y mañana en las calles
gracias eskerrik asko becerra jauna

señorías nuestro grupo también va a votar a favor de esta iniciativa hicimos una enmienda de esas enmiendas se ha sacado una enmienda de transacción que compartimos

nos suena quiero decirles que ya desde el año dos mil quince la comunidad autónoma vasca cuenta con una herramienta importante para frenar los impactos del cambio climático

tiene marca cinco premisas como condiciones esenciales a tener en cuenta en las políticas de cambio climático la primera

pública hoy en la iniciativa lo décimos promover impulsar y acordar iniciativas necesarias a fin de actuar

que se refleje la emergencia climática de manera transversal en los planes y programas y presupuestos que se elaboren en adelante

de la estrategia de cambio climático es impulsar

hacia una sociedad baja en carbono y adaptada apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico que permitan la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en todos los sectores y reducir

del territorio al cambio climático favorecer la corresponsabilidad de todos los agentes de la sociedad vasca en las acciones de mitigación y adaptación adaptar el conocimiento local sobre cambio climático a la toma de decisiones pero es que a esta iniciativa a esta herramienta que es la estrategia klima dos mil cincuenta se hicieron propuestas de resolución yo le voy a decir propuestas de resolución que se aprobaron

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a prever el recurso económico requerido anualizados en el periodo planificado

se ven afectados de inversión de promoción que estén vigentes actualmente y que tengan un vínculo con las líneas estratégicas que se pretenden

desglose de los recursos económicos destinados por líneas estratégicas y acciones identificando secciones programas

y otras tantas hasta noventa que se hicieron de mejora de esta estrategia por lo tanto

está reflejado en la estrategia de cambio climático lo que no

cambio climático ahora lo vamos a llamar emergencia climática me da igual pepe que josé josé que pepe lo importante es cómo marquemos las acciones y qué hagamos porque tenemos unos objetivos que se marcan en esa estrategia que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en euskadi al menos en un cuarenta por ciento para el año dos mil treinta y en un ochenta por ciento para el año dos mil cincuenta

alcanzar también para el año dos mil cincuenta un consumo de energía renovable del cuarenta por ciento

esta estrategia como le decía es la referencia para el resto de políticas y planes sectoriales del gobierno que tienen incidencia en el cambio climático y si importantes son las medidas y políticas de cambio climático

tanto o más importante es la coordinación de dichas acciones debido al carácter horizontal del cambio climático la coordinación de las estrategias y acciones de la participación de un número de agentes elaborando de forma efectiva por eso la propia estrategia establece la estructura de gestión y coordinación y como el otro día efectivamente en la comparecencia se puso en duda cuál era la estructura de gestión y de coordinación yo me he ido a la propia estrategia

establece la siguiente estructura el departamento de medio ambiente y política territorial del país vasco

con el apoyo e impulso principal de los departamentos de desarrollo económico y competitividad

y finanzas la viceconsejería de economía y presupuestos pero dice más dice que la dirección de medio natural y planificación ambiental es la

para ello deberá contar con la necesaria colaboración de todas las partes interesadas a efectos de elaborar la evaluación y seguimiento de la política climática que contará con el apoyo de la sociedad pública ihobe y de la agencia vasca del agua esta edición se encarga de apoyar

análisis diagnóstico planificación y evaluación de la política climática diseñada en esta estrategia además dice que adicionalmente se impulsará un mecanismo

para la implantación y seguimiento de las acciones de la presente estrategia pero cuando vamos a la fórmula de seguimiento y de evaluación también marca cuáles son

los informes de seguimiento los informes intermedios de evaluación y dice además que adicionalmente y en función de las necesidades

para complementar qué informes previos son necesarios serán coordinados por la dirección de medio ambiente etcétera

una estructura que ha funcionado probablemente no que tiene que funcionar sí pero esto es muy importante y le digo esto porque el otro día se puso en duda una cuestión señor otero en la justificación que usted hace a la moción hace referencia a que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático subió el tono en su informe del dos mil dieciocho

cambios en los sectores de la electricidad la agricultura el transporte y la industria

término e industria el transporte la gestión de los sectores de la electricidad y la agricultura la agricultura emite un tres por ciento es responsable de un tres por ciento

por lo tanto no podemos ponerlos en el mismo plano

el señor becerra a los atunes casualmente este verano los atunes casi no han tenido que salir los barcos venían a la costa y se subían prácticamente solos al barco

el informe aquí no ha pillado este hecho que marca otra tendencia no es que se alejaban es que venían a la costa solos o sea que

como les decía nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa somos conscientes de que los datos que tenemos sobre todo el año dos mil diecisiete no son buenos son malos

y han bajado otros consumos por lo tanto algo no estamos haciendo bien y que hay que revisar y que hay que

como le decía la estrategia de cambio climático tiene herramientas para modificar tiene herramientas

encomienda le hace esa estrategia a cada departamento por lo tanto si tenemos la estrategia tenemos las herramientas claras sabemos lo que hay que hacer lo que nos queda es darle un impulso más importante por eso nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda de transacción porque creemos que recoge lo que ya

estamos en un momento de dar impulso porque en nuestra acción creemos que no es la suficiente

un acuerdo amplio y necesario ante un tema que debe rebasar la voluntad y las buenas palabras para terminar con compromisos concretos y reales la preocupación por el medio ambiente por la mitigación de los gases efecto invernadero por la destrucción diaria del planeta y por innegable cambio climático es un asunto que ya lleva tiempo en primera línea de cualquier agenda política

y de las demandas presupuestarias de quienes gobiernan y de quienes están en la oposición pero es cierto que mientras todos los partidos políticos tratan el asunto

más concienciada las emisiones de efecto invernadero lejos de ser mitigadas han sufrido un repunte en euskadi tal y como reconocía la señora lópez de ocariz después de escuchar las intervenciones a lo largo de los últimos meses incluso las de hoy se pueden decir muchas cosas por un lado

que es justo reconocer cierta autocrítica y huir de la autocomplacencia los números hablan para lo bueno pero también para lo malo y el tiempo es cierto que corre en nuestra contra pero también es justo reconocer todas las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno vasco

actuando es cierto que todo no se ha hecho bien probablemente algunas cosas llegan tarde pero los datos es verdad que hablan y el compromiso de este gobierno no debiera de ponerse en cuestión y menos después de conocer la declaración institucional del gobierno vasco de emergencia climática

y desde luego comparto que hay que hacer acciones y que el gobierno debe protagonizar hechos y creo que se están haciendo esta declaración compartió el señor lehendakari con toda la sociedad vasca antes del verano ha sido una de las principales demandas de colectivos y organizaciones ecologistas y por el clima

un compromiso que dirige el señor arriola y que será el segundo proyecto de ley de cambio climático que llegará a esta cámara

en este gobierno es cierto pero tres años han pasado para todos porque el gobierno es verdad que tiene una responsabilidad que no tiene la oposición

la oposición también puede tener iniciativa política y una propuesta de ley de cambio climático también puede venir de la mano de la oposición si ustedes

las inversiones en una nueva era energética la movilidad sostenible políticas que debieran ser planteadas con una perspectiva de futuro

debiéramos afrontar la política de cambio climático como algo que supera las buenas palabras en las tribunas la transformación del modelo de desarrollo como una obligación porque señor

ni siquiera es una opción y usted sabe que no se puede dar un viraje de trescientos sesenta grados en una actividad económica porque sí

y detrás de esa hay muchas familias con empleos y hay muchas cosas que están de la mano y creo que es justo y responsable buscar

es necesario actuar en cuestiones ambientales y de transformación de nuestro modelo de desarrollo de nuestro modelo económico y del multilateralismo en particular desde la visión

ya no es cuestionado por nadie a diferencia de hace no demasiados años cuando algunos lo ponían en cuestión

y es obligación de la política ser capaces de dar respuesta sin olvidar la dimensión ética de este asunto porque también la ética en esto tiene su protagonismo

los gobiernos deben ejercer en plenitud su responsabilidad de lo que hagan o de lo que dejen de hacer se deriva obstaculizar o facilitar anticipar o retrasar las respuestas o las mejores soluciones para los problemas para la urgencia

ya no hay escusas porque estamos en un punto de no retorno y esto lo saben los jóvenes que están en las calles protagonizando las masivas manifestaciones

y desde luego los partidos que en cada momento están en la oposición la iniciativa que hoy nos trae el señor otero llega después de una interpelación en un pleno de control todos conocemos ya la posición del gobierno que además y no es baladí aprobó y presentó antes del verano

fue presentada por el lehendakari con todo su gobierno por tanto esto demuestra la preocupación por el asunto y el compromiso por aportar para lograr los objetivos marcados

de reproches sino de buscar y subrayar lo que compartimos más que lo que nos diferencia porque si entramos ahí probablemente quizás el voto no sería por unanimidad es importante reconocer la diferencia entre quienes gobiernan y gestionan y quienes desde su derecho legítimo como oposición no son capaces de reconocer lo planteado y lo comprometido porque es verdad que los datos de euskadi hablan pero también es justo reconocer que en euskadi no estamos igual que en otros lugares de españa estamos a las puertas

la oportunidad de negociar plasmar y lograr partidas presupuestarias concretas para luchar por lograr unos retos y objetivos medioambientales que no dejamos de repetir está ahí por tanto aprovechemos la oportunidad aprovechen ustedes la oportunidad desde la oposición

pero debiéramos superar el discurso y los votos a favor o en contra de los presupuestos en el cambio climático también pueden determinar el futuro de euskadi la enmienda acordada recoge las demandas planteadas inicialmente por quienes las firmamos compromisos y declaración de emergencia climática todavía nos queda mucho por hacer pero empezar acordando puede ser un paso importante y por último comparto con el señor becerra que hay que cambiar muchas políticas la política de energía creo que en este parlamento se aprobó un pacto para energía que se está trabajando fuera la política de residuos en este parlamento hemos tenido una ponencia que estamos

la política forestal de la que se ha hablado muchas veces y que a veces por competencias de diferentes instituciones no somos capaces de llegar a acuerdos y la política de movilidad con este parlamento también va a tener la oportunidad de debatir sobre una ley de movilidad sostenible

lo que se demanda el gobierno vasco está siendo capaz de traer alternativas aunque desde luego hay que trabajar por los consensos y los plazos y los tiempos como digo afectan a todos como le decía antes no comparto el tema de la emergencia climática

como es la estrategia que este gobierno vasco tiene sobre sus mesas para poder empezar a trabajar es cierto que hablar de emergencia climática es más que hablar de una estrategia yo creo que es importante que cuando el gobierno declara la emergencia climática sea también este parlamento quien pueda hacerlo por tanto concluir diciendo que los presupuestos están ahí la política se hace con partidas presupuestarias

a mi partido para hablar siempre del cambio climático de ese medio ambiente que durante mucho tiempo era casi

hablábamos todos pero que era difícil al final ser capaces de propuestas concretas porque hoy y se pudo ver en el último pleno de política general el medio ambiente tuvo un protagonismo en ese debate que no había tenido en los últimos años y probablemente nunca

actuar pero luego no busquemos excusas a la hora de no ser capaces de aprobar esas partidas presupuestarias que hacen realidad la política nada más muchas gracias

el propio nicholas stern que ha sido mencionado por el señor becerra reconozco el liderazgo que el país vasco tiene en el tema del cambio climático euskadi herri txikia da txikiak gara eta oso eragin txikia daukagu

la estrategia vasca de cambio climático que ya ha sido mencionada anteriormente clima

aprobada en dos mil quince y la estrategia energética dos mil treinta aprobada en dos mil dieciséis recogen el compromiso claro del gobierno vasco con los objetivos de reducción de emisiones y sobre transición energética planteando medidas estructurales y también urgentes de carácter integral y transversal

la emisión de gases efecto invernadero para el año dos mil veinte y la transición energética también ocupa un lugar prioritario en las políticas públicas con el reto de avanzar hacia

las emisiones a la cantidad en que puedan ser reabsorbidas y asumiendo ese objetivo de una economía con emisiones de carbono neutras para el dos mil cincuenta

la estrategia de cambio climático clima dos mil cincuenta consideramos que es una herramienta estratégica válida y en sintonía con los objetivos que marca la unión europea en esta materia

reducir la emisión de gases efecto invernadero en un cuarenta por ciento para el dos mil treinta y en un ochenta por ciento para el dos mil cincuenta y alcanzar un consumo de energías renovables

en el perfil ambiental de euskadi dos mil dieciocho que se publicó en el mes de febrero también podemos ver los resultados de las medidas que se han adoptado para la reducción de emisiones por sectores en el sector energético que representa un catorce por ciento de las emisiones totales

o el consumo de las energías que proceden de fuentes renovables pues ha aumentado entre dos mil quince y dos mil dieciséis en un doce coma cinco por ciento y la cuota de energía eléctrica que se genera de fuentes renovables pues alcanza en euskadi un catorce coma tres del consumo final

que genera el treinta y uno por ciento de las emisiones totales también ha visto reducidas esas emisiones en un cincuenta por ciento desde el año noventa

subía un sesenta y cinco por ciento pues las emisiones han descendido el sector del transporte que ha sido mencionado anteriormente es quizás en el que más atención deberíamos de poner porque es cierto que arroja peores resultados

una especial atención y también en el ámbito residencial la guía de edificación y rehabilitación sostenible para la vivienda pues recoge también una serie de buenas prácticas que harán que los edificios de vivienda sean más sostenibles medioambientalmente que

menoscaben ni la calidad ni la funcionalidad respecto al usuario final bi mila berrogeita hamar estrategia hau

lo importante es entender que tenemos un problema sistémico y que este sistema nos ha llevado a eso y hacer ver que muchas personas pequeñas

haciendo pequeñas cosas tenemos la ocasión de cambiar el mundo y en eso estamos eso buscamos cambiar el sistema pero es un proceso difícil y hace falta conciencia y para eso hacen falta acciones individuales uste dut

diecinueve millónes trescientos cuarenta y nueve mil toneladas de emisiones dos mil catorce diecinueve millónes doscientos ochenta y siete mil dos mil quince diecinueve millónes seiscientos sesenta y cinco mil dos mil dieciséis diecinueve millónes ocho mil y dos mil diecisiete hogei milioi berrogeita sei mila es decir

mayores emisiones de todo el tiempo de toda la era urkullu vamos a decirlo así se dan en los últimos datos eso quiere decir que la evolución es negativa eso quiere decir que estamos aumentando y no disminuyendo emisiones eso quiere decir que usted tiene que bajar aquí

lo bien que lo hemos hecho sino explicar lo que ha pasado porque la única interpretación correcta que se puede hacer de esto es que durante muchos años continuados las emisiones no han descendido sino

porque las estrategias no eran correctas porque el dinero que se ha puesto no es suficiente porque no hemos acertado en cómo se hace porque no le hemos dado la importancia suficiente por lo que sea pero tiene que partir de una autocrítica no de una denegación

es imposible pensar que tenemos que hacer cambios profundos beste kontu bat ere esan nahi dizut

un referente de exigencia a todos los países aunque algunos de ellos acuden a la cita de la onu con los deberes mejor hechos que otros

el gobierno vasco según la editorial del deia llega a la

con los deberes hechos llegamos con los deberes hechos emitiendo el doble que la media mundial emitiendo

no se explica no se entiende no se entiende no vamos a tener la ley de cambio climático los planes que usted una vez más ha alabado

cómo podemos decir con estos resultados en la mano que las cosas

bueno créame señora lópez de ocariz que yo me alegro infinitamente por nuestros arrantzales de que los bonitos entren solos al barco imagino que en las últimas semanas también las uvas de rioja alavesa habrán entrado solas a la kupela

el problema es cuánto tiempo pasará hasta que los bonitos decidan que se suben en otros barcos o que ya no se suben a ningún barco y ese es el drama en que hay que priorizar y usted tiene toda la razón de que no todos los sectores contribuyen igualmente al cambio climático y que aquí en euskadi tenemos un problema especial con la energía y con la movilidad

le compete al gobierno solo se aplica al gobierno necesitamos una ley que se aplique a todo el país a todos los sectores y a todas las instituciones y no la vamos a tener no la vamos a tener y ahí no me ha gustado que la señora roja apele a la falta de iniciativa política de la oposición

una proposición de ley de cambio climático pero hubiera tenido un informe desfavorable del gobierno diciéndome que se está haciendo una ley esperé dos años esperé dos años

y no es por culpa de la oposición que seguramente nos hubiera gustado tanto a mí

y eso no se puede achacar a la oposición eso no me ha gustado no pongo en cuestión el compromiso del gobierno el lehendakari se ha sumado a este debate sin embargo el consejero arriola

en ningún momento no sé los motivos pero no ha estado el día que debatimos sobre la emergencia climática hay un informe sobre la estrategia dos mil cincuenta la que se ha referido la señora lópez de ocariz hecha sociedad pública ihobe de las barreras y retos a los que se enfrenta la estrategia de cambio climático dos mil cincuenta primera barrera

la disponibilidad de fondos ha sido la dificultad mencionada en un mayor número de veces a la hora de implementar las acciones de la estrategia por eso cuando hablo de compromiso del gobierno lo ligo a los presupuestos

no pretende nuestro grupo que se den virajes de trescientos sesenta grados que por otra parte son los que da el gobierno porque trescientos sesenta grados reconózcame que es

y eso es lo que ha hecho el gobierno por ejemplo con la política forestal donde hemos asumido que los pinos se han enfermado por razones climáticas

del gobierno del país de las diputaciones ha sido pero vamos a seguir plantando pinos vamos a dar trescientos sesenta grados para seguir en la misma dirección tenemos un cambio de política energética y de movilidad donde ayer

adelantamos a un camión cisterna todo blanco que ponía

un oso polar y ponía debajo ecológico los últimos coches que ha comprado el gobierno vasco han sido de gas natural licuado no han sido eléctricos han sido de gas natural licuado esto a qué me lleva a que además de dar vueltas de trescientos sesenta grados lo que estamos lanzando a la ciudadanía son mensajes equivocados porque la ciudadanía si ve que el gobierno compra coches de gas natural licuado

mensajes erróneos y claro cuando apelamos y lo ha dicho la señora berasaluze a las acciones individuales

desde el gobierno desde las instituciones no se pueden seguir lanzando mensajes equivocados porque

a las acciones individuales es que cuando se le pregunta a la ciudadanía en todo el mundo si consideran que el cambio climático es un problema global

cuando se pregunta en euskadi solo dice que es un problema global el uno por ciento es decir a la ciudadanía vasca

de que efectivamente vamos por el buen camino y de que si damos un volantazo será para poner en riesgo el empleo y la actividad económica y por desgracia es justo
todo lo contrario eskerrik asko becerra jauna

cuestión yo no digo que la estrategia de cambio climático el fin de cualquier herramienta no no que es lo único que hoy tenemos y que no es malo que está bien otra cosa es cómo hayamos actuado cómo

se puso toda la parte presupuestaria porque entendíamos todos que necesitaba una parte presupuestaria

cómo ha evolucionado y de hecho bien no ha evolucionado porque los datos no dan bien y creemos que si se hubiese aplicado de manera más intensa con más conciencia hubiese avanzado mejor pero sí tienen herramientas para coordinación con las distintas administraciones tiene herramientas

se impulsará un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las distintas administraciones de la comunidad autónoma de euskadi para la implantación y seguimiento de las acciones de la presente estrategia pero es que además

contará en todo momento con mecanismos de participación ciudadana de agentes socioeconómicos habla de procesos de dinamización

herramientas que tiene de participación ciudadana por lo tanto no incumbe exclusivamente

eso es lo que pone en la estrategia quiero decir la estructura está perfectamente marcada otra cosa es cómo se ha desarrollado y bueno nosotros impulsamos en

la ley de cambio climático y el señor leopoldo barreda con otros miembros del equipo aquel proyecto de ley que llegó a la cámara incluso se trabajó haciendo enmiendas

pero desde luego estábamos ya concienciados plenamente de que tenía que venir una ley de cambio climático a esta cámara o sea no nos hemos desayunado ahora

y de impulso otra cosa es las circunstancias que se has dado por lo tanto

en cuanto al cambio climático y las acciones que vamos a desarrollar y que impulsaremos

gracias presidenta y seré muy breve la verdad señor becerra no entiendo para qué

a un acuerdo por unanimidad en un tema que parece que todos compartíamos más o menos sin entrar al detalle como le he dicho en mi primera intervención bueno al final a usted le parece que todo se ha hecho mal que estamos mandando mensajes equivocados a la sociedad

que cuando utilizamos esta cámara para no traer las leyes

iniciativa de la oposición lo que le he querido decir no es que ustedes hagan poco o mucho o regular

la oposición ha entendido que era urgente y determinante la necesidad de traer una proposición de ley y lo han hecho como por ejemplo en el tema de los establecimientos comerciales

ni que lo hacen mejor ni que lo hacen peor sino que hay una gran diferencia entre los partidos que tienen responsabilidad de gobierno y que gestionan y que la dificultad llega cuando te tienes que poner a tomar determinadas decisiones que afectan a unos y a otros porque usted decía no los trescientos sesenta grados se ha hecho para no hacer nada usted sabe que eso no es cierto

se han tomado muchas decisiones en lo que tiene que ver con políticas que acaban afectando al cambio climático que sabe como le he dicho está la ley de movilidad sostenible que es algo que se reclamaba

se acabó incluyendo una parte de transporte que no estaba inicialmente porque el gobierno entendió que había áreas que no tocaba el proyecto de ley inicial que era necesario

a los ciudadanos a nivel personal cada uno en su casa y como es lo que tenía que ver con el transporte

probablemente todo no se ha hecho bien yo soy la primera que he dicho que creo que hay que ser autocríticos

tenemos mucho en el debe en lo que tiene que ver con el cambio climático pero creo que tampoco es justo determinadas afirmaciones cuando se le pregunta a un ciudadano vasco

que lo considera un problema perdone señor becerra pero eso no es responsabilidad del gobierno vasco en mi opinión

qué percepción tiene de la mejora de la economía en euskadi y responde que está mucho mejor que hace siete años me gustaría escuchar en esta tribuna que eso también es responsabilidad del gobierno vasco

la culpa es de lakua y cuando la respuesta nos gusta es

depende en qué momento probablemente si esa pregunta del cambio climático se le pregunta hoy a la ciudadanía vasca con la huelga en la calle con lo que está pasando

con todo lo que está movilizando la gente joven en la calle probablemente la respuesta

y el momento que se pregunta y cómo se pregunta es determinante pero sinceramente ese uno por ciento no es responsabilidad del gobierno vasco

porque todos los partidos políticos unos porque tenemos más historia y otros porque tienen menos

y cuando ha llegado la hora de sentarnos en las mesas de negociación no hemos sido capaces de pactar usted lo sabe igual que yo porque hemos vivido una ponencia muy larga de residuos

y cuando llega la hora de vamos a sentarnos a poner cinco guiones

es mucho más complicado de lo que parece pero me quiero quedar con que

una enmienda entre todos porque entendemos que la preocupación es común

me avisa de que van a estar responsablemente en el tema de los presupuestos con lo que tiene que ver con el medio ambiente

no tenía la menor duda pero además de las partidas presupuestarias ser capaces de negociarlas para votarlas a favor

pues sinceramente señor otero vale de bastante poco eskerrik asko

berak esan zuen que hay que dar un volantazo beno zuk ere

ginatekeela y yo creo además que es evidente que se ha desligado

ha crecido la productividad y han disminuido las emisiones yo creo que las medidas que se han tomado algún resultado bueno han dado con lo cual las medidas malas tampoco

es verdad que he mencionado las palabras del joven jon kareaga que hablaba de esas acciones individuales en espacios pequeños cosas pequeñas y es verdad que la ciudadanía se tiene que implicar todos nos tenemos que implicar y para eso sí es cierto

y hacia dónde queremos ir pero sin alarmismos en eso creo que también coincidimos todos y con veracidad y compartiendo todos creo

cuál tiene que ser esa información porque también si nos vamos a dedicar a

los datos comparativos hay que cogerlos respecto a no sé qué año y también si eso lo utilizamos para

estoy de acuerdo en que hay que informar de que hay que contar la verdad pero sin alarmismos y sin mentir eskerrik asko

lo hacemos en este parlamento con el primer pleno ordinario de este periodo de sesiones son varias las iniciativas que hemos traído a debate en la que apostábamos

pública de calidad que garantice la equidad educativa como única opción que puede asegurar que el derecho a la educación

que genera cohesión social ofreciendo una enseñanza de calidad para todo el alumnado independientemente de sus condiciones económicas resumiendo

garantizar la equidad educativa garantizar la igualdad de oportunidades una serie de garantías que desde elkarrekin podemos vemos necesarias para conseguir

el periodo de matriculaciones del alumnado en los centros educativos es un momento clave para el desarrollo personal futuro no solo de ese niño o niña sino también para el futuro de la sociedad

la vasca en la que la tasa de natalidad se reduce a pasos agigantados y la falta de cohesión social es palpable en muchos espacios de nuestra vida diaria el centro escolar en el que cada familia decide matricular a sus hijos e hijas directa e indirectamente

y social tipo de relaciones hábitos etcétera y esto es sumamente importante cuando nos encontramos ante un sistema educativo sustentado en dos redes prácticamente equilibradas con un cuarenta y ocho por ciento la red privado concertada y un cincuenta y uno por ciento la red pública

por escuelas públicas e inclusivas para todas y todos sin distinción porque todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad independientemente de su índice socioeconómico y cultural su origen

la escuela no puede ser un elemento que cree brecha social ni el origen de que la sociedad vasca navegue a dos velocidades en este sentido

que llevan a las familias a matricular a sus hijos e hijas en unos u otros centros educativos cuántas familias lo hacen por el proyecto educativo deberíamos salir a la calle a preguntar a los padres y madres cuál es el proyecto educativo del centro al que acuden sus hijos e hijas y pocos sabrían explicarlo

y no tenían respuesta pero sin embargo si se quejaban de los ratios de treinta alumnos y alumnas en sus aulas frente a los veinticinco de la pública porque sí consideran sin embargo

elemento que incide en la calidad educativa y que solo ofrece la escuela pública entonces cuál es la razón real por la que las familias acuden a la escuela privado concertada

y desde luego esto que hoy en día es una panacea

a todas las familias deben evitarse todo tipo de barreras que puedan condicionar a las familias a elegir unos u otros centros

las posibles barreras lingüísticas o las faltas de recursos necesarios para el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo etcétera etcétera es por ello

asegurar el acceso a la escolarización de todo el alumnado en condiciones de oportunidades medidas que garanticen la gratuidad en la educación obligatoria tanto en centros públicos como privados concertados dirigidas al alumnado procedentes de familias con renta baja de modo que no exista pago alguno para que estas familias por la educación obligatoria reglada

el control de las cuotas voluntarias para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares estableciendo importes máximos a las mismas

establecer mecanismos que obliguen a todos los centros educativos a realizar un esfuerzo compartido y equitativo en la atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo más recursos y apoyos para los centros que se encuentran en situaciones

estas son algunas de las demandas que se vienen reclamando medidas encaminadas a acabar con la segregación escolar causada por el índice socioeconómico de las familias y ser este uno de los factores de la euskadi como decía de las dos velocidades en este sentido y como ya he dicho al inicio de mi intervención desde elkarrekin podemos venimos registrando diversas iniciativas que abordan el complejo de la segregación por ejemplo

sostenidos con fondos públicos y hoy nos toca esta relativa a la garantía del derecho de escolarización de la escuela pública vasca

que se perciba con normalidad que euskadi sea uno de los territorios de europa que más subvenciona la enseñanza privada

haciendo efectivo los principios de gratuidad de la enseñanza de inclusión de equidad y compensen las diferencias extracción social del alumnado que componen unos u otros centros de nuestro sistema educativo

es el rechazo a la mezcla social porque más que hablar de libertad de elección deberíamos hablar de opciones ilimitadas

que le corresponde por su origen social y no podemos permitir que las escuelas sean

sociales existentes y no es algo que digamos solo nosotras el propio consejo escolar de euskadi en sus informes periódicos sobre la situación de la enseñanza en euskadi aporta interesantes datos sobre la desigual distribución

del alumnado inmigrante del alumnado con necesidades educativas especiales del alumnado repetidor del alumnado que no está en el nivel

y en el último informe referido al periodo de dos mil quince dos mil diecisiete

superior a cualquiera de los estratos de la red pública con la correspondiente repercusión en los resultados académicos y también en las puntuaciones de las evaluaciones externas

o las evaluaciones de diagnóstico pues es de sobra conocida la correlación entre condiciones socioeconómicas y rendimiento académico

y es esto lo que está derivando a las familias a la red concertada y no

a tenor de estos datos el propio consejo escolar en euskadi ha venido realizando propuestas relacionadas con la equidad y entre ellas la necesidad de asegurar la gratuidad

o como que las cuotas por actividades complementarias sean aprobadas por la administración exigiendo en definitiva lo que ya está consagrado por ley y que pedimos en el punto cuatro de nuestra transacción a la que hemos llegado hoy porque hoy hemos conseguido firmar el siguiente acuerdo por todos los grupos de esta cámara instando al departamento de educación

inclusiva equitativa e innovadora de calidad para lograr un mayor equilibrio cohesión social interculturalidad y convivencia en nuestros centros educativos

iniciales haya una valoración de proyecto educativo y se priorice

a establecer mecanismos para que todos los centros educativos y entidades de entorno hagan esfuerzos compartidos y equitativos en la atención a la diversidad del alumnado

y proyecto educativo que quieren para sus hijos e hijas continuar con la actividad de inspección desde las comisiones territoriales como desde la inspección educativa para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de las personas

debo agradecer el esfuerzo y voluntad por llegar a un acuerdo que orienta el trabajo hacia el fortalecimiento de un sistema educativo donde la escuela pública
es clave para una sociedad de futuro mila esker eskerrik asko macazaga

señorías lo primero que querría destacar es que nos encontramos

analizando una pnl que entró por registro prácticamente hace un año

desde luego es de dos mil dieciocho luego esa urgencia que la proponente la señora macazaga nos explicaba porque presentamos muchas

pero no importa sigue teniendo actualidad todo lo que se refiere a la educación sigue

tengo que decir que cuando la leí por primera vez vi

que pudiéramos llegar al consenso que hemos alcanzado y el consenso desde luego es de agradecer

detrás del consenso alcanzado hay posturas bastante diferentes y lo hemos visto ahora en la intervención de la señora ubera sobre todo

y yo me identifico con ella la escuela pública tiene una gran calidad

y es cierto que al ser plural es compleja de gestionar pero yo también huiría

una visión catastrofista de lo que es la escuela pública porque no es cierto entonces vamos a ver yo creí que era difícil

que no se cerraran aulas públicas mientras hubiera aulas concertadas que tuvieran suficiente alumnado la verdad yo me quedé bastante harrituta qué quieren decir

a trasladarse a la pública o que nos vemos obligados a mantener aulas públicas aunque solo haya dos o tres niños era una postura que sin más explicación

que fueran niños a la concertada hasta que no estuvieran esas aulas públicas aseguradas pues

y perdonen si estoy haciendo un juicio de intenciones pero es que ante este encabezamiento

no podía hacer otra cosa y luego también decían cosas como que el origen de la escuela concertada era la falta de plazas en la pública mire eso no es cierto

el origen de la escuela concertada está en tradiciones de este país que vienen yo creo desde finales del dieciocho primero por una parte

las opciones religiosas normalmente católicas tuvieran

ha sido siempre así y luego por ejemplo tampoco nos podemos olvidar en lo que se refiere a la formación profesional las escuelas sindicales

que durante la república y antes eran unos sindicatos que tenían una libertad

vertical pero las había las había y llegó la democracia y vimos que hubo padres que decidieron

para tener una seguridad sobre

cómo funcionaban sus hijos en la educación y hubo otro sector que querían impulsar el euskera de una manera

muy fuerte y se crearon las ikastolas e incluso cuando el modelo quinientos se impuso esas ikastolas desearon seguir existiendo y luego

quisieron seguir formando a los alumnos en el humanismo cristiano

y dicen no porque no había sitio pues no es que eso no es verdad eso es desconocer nuestra propia historia luego también ustedes

la atención con qué desprecio habla usted de la libertad porque la libertad de elección es una excusa porque se dice la libertad de elección para no sé qué pues no mire

en educación y en todos los ámbitos es una de las cosas más importantes que hay y está protegida en todo nuestro ordenamiento y la libertad de educación no solamente en la constitución sino en ámbitos muy superiores desde

universales o declaración de derechos humanos etcétera etcétera

y una excusa es uno de los pilares en los que se sostiene una convivencia civilizada

a elegir la educación de los hijos y luego es que a veces ustedes hablan de que tiene que haber una cohesión social

pero se conseguirá con una uniformidad educativa porque ustedes

uniformar a todo el mundo por el mismo patrón no es que

ahora cuando llegamos a la práctica uniformidad qué más diversidad hay que haya distintas maneras de educar a los hijos pero con una cosa muy importante que es el control de la administración o sea aquí hay unos básicos que todo el mundo tiene que cumplir usted dice que aquí se subvenciona más que en ningún sitio miren no es exactamente una subvención yo diría aunque no literalmente en sentido jurídico que es una encomienda de gestión una encomienda de gestión

y esa encomienda de gestión lógicamente supone una transferencia

económica pero supone también la imposición de normas la imposición de criterios

es decir que el hecho de que haya esta diversidad

indicamos que es el adecuado aquí no concierta cualquiera para concertar

baremos hay que cumplir criterios hay que cumplir currículums y eso hace lo público tenga dentro de esos cauces en los que permite la diversidad pero consiga lo que usted quiere esa cohesión social y esa inclusividad y luego aquí hay puntos

y que la verdad para nosotros tiene otro cómo no si usted nos dice y el consejo escolar vasco nos dice

cómo no los vamos a priorizar pero es que ustedes esto lo plantean como una guerra

y nosotros no nuestra preocupación es tanto la concertada como la pública y por eso precisamente por eso priorizamos aquellos centros

el consejo escolar vasco nos dice que son la red pública vamos a volcar todos nuestros esfuerzos vamos a volcar

porque como hemos dicho muchas veces la educación es el motor de la movilidad social la educación es la que consigue

se lo he dicho varias veces que el hijo o la hija de padres

y que la hija o hijo de padres adinerados no tenga garantizado el futuro adinerado la movilidad social eso es lo que buscamos para que todo el mundo pueda prosperar y entonces a mí si el consejo escolar vasco me dice dónde hay más dificultades para conseguir eso

se va a volcar porque para nosotros la perspectiva es los niños y las niñas de euskadi que son

y es el futuro de euskadi y nos da igual que vayan a la concertada que vayan a la pública que elijan ellos pero donde haya dificultades nuestro grupo el grupo popular

que hace tiempo pedimos nuestro grupo pidió a la consejera que no podemos resolver estos problemas que nos vienen encima a golpe de pnl o a golpe

fantásticos no necesitamos y lo repito otra vez aquí un estudio

demográfica de la incidencia de la evolución demográfica en la educación para los próximos diez o quince años se lo pediré a la consejera cada vez que uno de estos temas surja porque si no estaremos así que no

mientras haya la concertada que no sé qué no sé cuántos no necesitamos una proyección de la cual nos desviaremos sin duda
pero por lo menos tendremos una idea a diez o quince años muchas gracias eskerrik asko

bueno se cumple una máxima en este parlamento cada vez que hay una propuesta firmada por unanimidad más se empeña cada partido político en manifestar las diferencias que les separan de ese supuesto acuerdo pero en fin yo creo que al final debe de prevalecer el acuerdo bien los socialistas siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo

y garantizando a todos una igualdad de oportunidades los centros privados concertados aquí supongo que habrá diferencias de opinión sobre este tema nacen con la democracia cuando el sistema público se expande de tal forma que resultaba insuficiente

desde mediados del diecinueve se ha venido instaurando en españa centros escolares privados

de crear centros educativos públicos fue con una ley

en la que se establecía el criterio de que allá donde no llegasen los centros públicos el estado podría financiar centros privados

y que funcionaran bajo los criterios de gratuidad y no segregación en la admisión del alumnado ese de esa declaración de principios es la que inspira en gran parte lo que hoy

de ese modo muchos centros privados se fueron convirtiendo en centros concertados

y debemos de reconocer que la escuela pública vasca tuvo una gran mejora tanto cualitativa como cuantitativa

por ello siempre hemos trabajado por su mejora y lo vamos a seguir haciendo para que siga siendo el eje y el centro del sistema educativo vasco nosotros lo tenemos claro la formación desde la infancia y hasta el final de la vida laboral es el eje troncal

la cabeza el liderazgo de euskadi y subirnos definitivamente al tren del siglo veintiuno y nuestra obligación es defender y garantizar el derecho a la mejor educación pública de calidad que tienen todos los niños y niñas garantizando una oferta pública suficiente en todos los niveles y modalidades educativas

y que ofrezca igualdad de oportunidades nuestro objetivo es muy claro

remitido en varias ocasiones y es promover un gran pacto educativo que culmine con una nueva ley vasca de educación en la que se reconozca el papel esencial de la escuela pública

pero entendemos la realidad de nuestro sistema educativo el vasco me refiero y el derecho que las familias tienen de matricular a sus hijos e hijas en un determinado centro escolar y lo que no podemos permitir es que exista ninguna brecha entre redes ni entre centros educativos de la misma comunidad hay que establecer por eso bases regulatorias para la financiación del conjunto del sistema porque no pueden existir desigualdades entre los dos modelos educativos y una cosa tenemos clara

tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y cada vez se va notando que esa desigualdad entre ambos modelos el público y el privado están aflorando cada vez es mayor el peso que soporta la escuela pública en matriculaciones de extranjeros por ejemplo que la concertada

algunos centros de la red pública y aquí debiera de haber una equidad entre ambas redes que por desgracia no se da por muchos motivos

en los que el setenta por ciento del alumnado en algunos casos sea extranjero como se está dando eso no es integración ni de unos ni de otros el nivel de las clases no se debe adecuar siempre al nivel de los alumnos sino al revés los alumnos tienen que tener los medios y la capacidad y los recursos para seguir

es nuestro deber por tanto luchar contra la segregación y la exclusión social y trabajar por la inclusión la integración y la igualdad de oportunidades nos postulamos a favor de esta lucha de una sociedad sin segregación

debe ser la herramienta para canalizar esta brecha social pero evidentemente también se necesita la ayuda de la concertada los cambios que se han producido en los últimos años en nuestro entorno cambios culturales cambios socioeconómicos han dibujado una sociedad

y en este contexto la política educativa debiera de ser el motor el factor que interviene en el fomento de la cohesión social promoviendo una intervención que con un carácter inclusivo

y por eso se deben de tomar medidas que impulsen y ayuden a la integración del alumnado con políticas públicas de calidad y además eficaces porque el tema de la segregación es muy sensible y merece mucho trabajo para alcanzar soluciones y otro punto son

pero más importante que eso solamente es su eficiencia y su eficacia porque hemos podido comprobar que en otras comunidades con menos recursos económicos

y hay que trabajar para alcanzar un punto óptimo tenemos un sistema educativo potente con expectativas

para no caer en un sistema de dos velocidades es verdad que hay muchos problemas

hay que seguir trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades y para garantizar la escolarización en términos de igualdad y calidad para todo el alumnado de la comunidad autónoma de eso

y seguir trabajando con todos los agentes educativos buscando siempre avanzar en un sistema público plural inclusivo y de calidad y eso requiere también un profesorado bien formado

por eso son tan importantes las ofertas públicas de empleo porque garantizan entre otras cosas la estabilidad del sistema educativo y reducen la tasa de interinidad por ello

equitativa e innovadora de calidad para lograr un mayor equilibrio cohesión social y convivencia teniendo como eje central como todo el sistema

debemos de mejorar la calidad del sistema educativo avanzando en una mayor y más eficiente gestión de los recursos teniendo al alumno en el centro del sistema educativo

de oportunidades probablemente el texto de hoy no satisfaga los máximos de ninguno de los partidos políticos que estamos en la cámara por eso se trata de una enmienda transaccional

que es absolutamente esencial encontrarlo en un tema tan transcendente

como es la educación y ese mismo espíritu de alcanzar un mínimo común denominador es el que debiera inspirar también la puesta en marcha de la nueva ley de educación
muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

y por el contrario se carece de una apuesta firme por la escuela pública ikusi besterik ez daude zenbaki eta datuak objetiboki hori egia

los servicios públicos esenciales entre los que destaca de manera muy importante la educación debe seguir dotando de financiación suficiente al departamento de educación de manera que siga avanzando

hay que avanzar en cuestiones que ya se han mencionado aquí como las becas para impulsar la igualdad en el acceso a la educación la modernización tecnológica y pedagógica

medidas que favorezcan un mayor equilibrio cohesión social interculturalidad convivencia en los centros

como había acuerdo de todos los grupos no pensaba intervenir pero sí que quiero aclarar que desde luego si eh bildu tenía

sabrán los complejos que tiene eh bildu en relación a su defensa en la pública elkarrekin podemos no tenemos mochilas y por encima de todo vamos

escuela pública vasca pensábamos que esta era la primera iniciativa que se hacía en relación a la educación y que era importante que todos y todas estuviesemos de acuerdo con instar en que la escuela pública debe ser el eje de la educación pública la educación del sistema educativo vasco

únicamente ha mostrado una fotografía en blanco y negro de la educación del siglo dieciocho mila esker eskerrik asko

que dice que he hecho un relato una fotografía en blanco y negro del siglo dieciocho yo me refería más bien al siglo diecinueve y el problema es que en aquella época no había fotografía en color aparte de eso me voy a limitar a leer lo que guía nuestra actuación en este tema y yo creo que en todos estos temas en este parlamento vamos a ver el artículo veintisiete uno de la constitución dice uno todos tienen derecho a la educación se reconoce la libertad de enseñanza y cuatro

es obligatoria y gratuita y quienes se crean que esto es una especie de cosa que se le ha ocurrido a los padres constituyentes

las legislaciones tanto estatales como internacionales y así mismo nos basamos en el artículo dieciséis del estatuto que dice de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la constitución es de la competencia de la comunidad autónoma del país vasco

niveles y grados modalidades y especialidades sin perjuicio del artículo veintisiete de la constitución

y de las leyes orgánicas que lo desarrollen y de las facultades que atribuye al estado

pero solo quiero decir que en los textos fundacionales

de la constitución que no es una rareza porque ocurre en todos los países como de nuestro estatuto la palabra que aparece siempre es
la libertad de educación gracias eskerrik asko

hace algunos meses este parlamento aprobó que el derecho a la educación en cuanto a derecho universal lleva a considerar la educación como un bien público

la convivencia la cohesión la calidad etcétera y someterse a normas comunes y tanto ese derecho universal de la ciudadanía a recibir una educación de calidad y la correspondiente obligación institucional de hacerlo efectivo

han de ser desarrollados a través de políticas educativas eficaces que nos permitan una sociedad más justa solidaria y democrática identificando todo ello

público fundamental nuestro grupo cree que debemos seguir apostando decididamente por ese sistema educativo desde todos y cada uno de los centros

jardunda eta benetan uste dut oso oker dabiltzala nuestro grupo reconoce que el sistema educativo vasco parte de un consenso previo

y en ese sentido nosotros animamos al gobierno vasco para que siga trabajando en la vía del acuerdo que garantice una ley de educación adecuada a los tiempos

que defina los objetivos los principios y los valores que deben guiar el sistema educativo vasco del futuro erdibideko bat adosteko gai izan gara

egun on señora presidente señorías consejera

la iniciativa que presentamos no me voy a extender mucho es una cuestión concreta

inquietud de la preocupación que este grupo parlamentario recogió en julio a través de padres de alumnos

matriculación de formación profesional en bilbao en concreto en el

y en relación también con los modelos lingüísticos a implementar en relación con los ciclos de formación profesional estamos ante una proposición no de ley que tiene que ver con la capacidad de elección con la libertad de

lingüístico como es con la libertad de elección de centro o la libertad de elección de estudios

de ciclo de lo referido en este caso a la formación profesional un debate que ya hemos tenido en otras ocasiones en esta cámara

la deficiente organización de un sistema que limita la capacidad de elección de los padres

sobre la educación y sobre los modelos presentamos la iniciativa en el mes de julio en aquel momento conocimos el hecho de que varias decenas de alumnos de formación profesional del centro zabalburu centro concertado se quedaban

superior de logística y transporte a favor de una sola aula del modelo b cuestión no deseada por los alumnos que optaban

el criterio de hacer solo un aula el modelo b cuando había demanda mucho mayor

modelo a y cuando existía capacidad por profesorado por instalaciones de organizar las dos aulas según la información

establecimos unas preguntas unas solicitud de información al gobierno vasco en relación con estos extremos y según la información del propio gobierno vasco la señora consejera

zabalburu se presentaron sesenta y nueve solicitudes en modelo a sesenta y nueve y veinticuatro

es decir casi tres veces más en a que en b tres veces más y solo se organizó un aula el modelo

y otra es actuar de esta manera tan desproporcionada en perjuicio de los alumnos que elijan de una manera masiva el modelo a para logística y transporte en este caso en el centro zabalburu

eso sí como es centro concertado no se apoya la creación de un aula del modelo a sí se hace

pero no en el centro concertado de bilbao habiendo tres veces más el triple de solicitudes para modelo a que para modelo

concertado de bilbao y eso desde nuestro punto de vista como planteamiento con esta situación objetiva pues no está bien habría posibilidad había posibilidad hay posibilidad

para pensarlo para próximos cursos hay posibilidad porque hay posibilidad

porque esto no está bien esto no está bien es un tratamiento injusto es un tratamiento discriminatorio y desproporcionado en relación con esta realidad con esta titulación con este ciclo con este ciclo de la formación profesional concreto de logística y transporte

y además es que seguro que este tipo de actuaciones que no son realistas que no forman parte de las necesidades

a la hora de su formación profesional va en contra de los mejores resultados sin duda académicos de la búsqueda de una educación de calidad estas cuestiones que son organizativas pero que se desencadenan de esta manera van en contra de los sistemas de los parámetros de calidad e incluso de la vinculación del alumno leíamos en un medio de comunicación en julio que algunas personas habían decidido venirse

que matriculara al hijo en santander y en otros centros fuera de la comunidad autónoma vasca en relación con esta cuestión y había posibilidad de haber hecho eso

con esa petición tan grande

y en zabalburu había demanda había demanda efectivamente ahí se les complicó la situación a alumnos a padres

con instalaciones con posibilidades es decir

debe tener garantizado su derecho a elegir libremente la educación que quiere para sus hijos

elegir con las mínimas limitaciones el centro el modelo en que se quiere que estudien los hijos además

por nuestras normas por la constitución por el estatuto ampara el derecho de los padres y madres a decidir por el tipo de educación que se quiere para sus hijos la ley de escuela pública vasca reconoce el derecho de los padres y madres

así como la obligación de los poderes públicos de la comunidad autónoma del país vasco en el desarrollo de los mecanismos administrativos que garanticen la libertad de esa elección es decir estamos hablando de una cuestión puntual pero es así pero es general también el problema

y los ciudadanos que la conformamos representamos una realidad lingüística diversa en la que se pueden encontrar distintas realidades

por ello es prioritario defender la libertad de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca al recibir la educación que decidan libremente y ese es un caso puntual pero es un caso

las cuestiones de formación profesional no se empezaban a dar no se estaban dando

limitaciones estos problemas con los modelos con el modelo a pero

que podía poner en funcionamiento empezamos a encontrar trabas en relación con la aplicación con la organización de la formación profesional tras la finalización del plazo de prematricula hemos visto y hemos tenido constancia como decíamos antes

del colegio zabalburu de bilbao se ha decidido únicamente el modelo b aunque había peticiones suficientes para formar otro grupo más el modelo a como ocurría en el centro de portugalete es decir esa es la realidad

esperando y pensando que esto se puede arreglar y que se debe arreglar

con estas magnitudes que hemos visto vuelvo a decir el colegio de zabalburu concertado

modelo a que el modelo b en el centro repelega

en a había noventa y ocho casi casi cien en b hirurogeita bederatzi en bostehun hogeita hamar es decir lógicamente en el otro sitio es que había el triple es hay que favorecer era concertado pues había que favorecer porque hay mecanismos que la propia

la viceconsejería de formación profesional puede tomar decisiones para que estas cuestiones se organicen y se hagan está claro que ya hemos visto que hay una enmienda de totalidad

de esta situación de esta cuestión concreta de este colegio de esta situación en relación con el modelo a

planificación lingüística en la formación profesional y respetando la estructura del modelo lingüístico

siga atendiendo en la medida que haya la demanda existente en modelo a es que aquí no se ha hecho

vamos a ver cómo evoluciona esta situación

para que el año que viene sea el triple de alumnos que exijan o que pidan el modelo a pues se queden otra vez ante un problema de estas características

y no tener que desplazarse a otros sitios o cambiar injustamente de ciclo de formación profesional

hay posibilidades estamos hablando de unos estudios logística

con necesidades en muchas empresas todas las conocemos grandes superficies

entonces tiene que cambiar porque no hay modelo a en el centro

nosotros lo entendemos como un desequilibrio como una desproporción

si no se aprueba la iniciativa pedimos por lo menos que haya una reflexión por parte del departamento ya veo que le interesa a la señora consejera el tema

se lo trasladaremos y desde luego seguiremos apoyando a esas familias a esos padres a esos alumnos

iniciativas al respecto ahora nos toca una proposición no de ley presentada por el grupo popular relativa al colegio zabalburu que es un centro de formación profesional como ha dicho el señor barrio que además de impartir bachillerato

por lo que no nos podemos ajustar ni regir por la ley de escuela pública vasca sino por la ley cuatro barra dos mil dieciocho de formación profesional del país vasco que es la ley que atañe en este caso pero bien es cierto que los poderes públicos tienen que garantizar los mecanismos suficientes para la libre elección del modelo lingüístico de alumnos y alumnas uno de los principios educativos de este centro

es favorecer el uso normal y no discriminatorio de las dos lenguas oficiales fomentando la integración de cada persona en su entorno sociocultural

porque el avance de las lenguas cooficiales el avance del euskera y el castellano tiene que ser complementario para ello han de garantizarse el uso de ambas lenguas expresándolo en la libre elección democrática

lo que tenemos claro es que la lengua no debe ser nunca obstáculo ni impedimento para el aprendizaje y estudio de cualquier curso ciclo o etapa escolar para ningún alumno o alumna nuestro estatuto de autonomía recoge en su artículo seis que el euskera lengua propia del pueblo vasco tiene el carácter de lengua oficial en la comunidad autónoma

a conocer y a usar ambas lenguas es decir toda persona tiene derecho a usar libremente el idioma que prefiera para su desarrollo educativo y profesional por ello no debería darse en ningún caso en ninguno de los dos idiomas

y podemos elegir en qué idioma nos desarrollamos se debe garantizar de manera efectiva y real el modelo en el que quieran que sus hijos estudien incluso

es decir garantizar de forma efectiva la elección del modelo lingüístico cuando haya demanda suficiente

analizando con objetividad si existe la posibilidad o no dependiendo de la demanda real existente para establecer el modelo que se imparte para un determinado ciclo si se imparte en los dos modelos o solo en uno de ellos pero lo que está claro es que hay buscar mecanismos y alternativas para que se pueda optar con garantía al idioma en el que se quiera estudiar porque siempre ha de ser viable y siempre que haya una demanda esté contrastada y sea suficiente entendemos que tenemos dos lenguas oficiales

no debieran verse obligados a una insuficiencia para responder a sus demandas

no debieran ser cuestiones políticas sino pedagógicas la configuración del sistema educativo tiene sus características

como tal por ello hemos presentado la siguiente enmienda con el partido nacionalista vasco en la que instamos al gobierno vasco

garantice la presencia normalizada de la lengua vasca en el sistema de formación profesional dando así aplicación a las disposiciones generales en materia lingüística

y por último que en el marco de la planificación lingüística en la formación profesional y respetando la estructura de modelo lingüístico de cada centro en este caso del colegio zabalburu siga atendiendo en la medida en que la haya la demanda existente en el modelo a lo sorprendente señor barrio es que teniendo una tremenda preocupación

para intentar una aproximación o llegar a una enmienda transaccional es como si quisiera usted salir a la tribuna y venderles el producto a alguno de los padres para decirles el capitán trueno de la defensa de sus derechos he sido yo

porque si no no entiendo si usted tiene esa preocupación tan enorme sobre lo que ha pasado por qué no se ha dirigido ni al partido socialista ni a ningún otro partido de la cámara

para cruzar algún texto no hemos sabido nada de usted hasta este momento hasta el que ha subido usted

mucho me temo que más allá de la preocupación razonable por algunos de los padres

una cierta tendencia a ponerse una medallita con este tema y sinceramente en estos temas me parece que es bastante triste eskerrik asko pastor jauna

señor barrio la consejera la que usted dice que no le interesa la formación profesional está en estos momentos en bruselas en una de esas reuniones a las que nos convocan a euskadi por ser pionero o pionera

en la que europa está muy interesada en lo que hacemos pero por comenzar comencemos por los hechos y contemos todos los hechos como son

usted conocerá señor barrio que existe una orden

que es la que planifica todo lo relativo a los concertados y en base a esa planificación también se planifica los ciclos los cursos que cada uno va a dar en modelo bilingüe

nadie va obligando son los centros los que eligen en qué modelo lingüístico van a impartir

los ciclos y en este caso el centro de zabalburu

bilingüe entre euskera y castellano es cierto que había una demanda importante de modelo a y usted conocerá que

los peticionarios de modelo a tienen un perfil lingüístico digamos heterogéneo

que tiene capacidad para poder recibir también esos cursos en un modelo bilingüe lo que se hizo fue invitar

a que se apuntaran

y al resto se les ha encontrado en el centro de repélega de portugalete su acomodo en el ciclo logístico y transporte que pidieron y en base

al modelo lingüístico que eligieron porque nosotros

claro por qué no ha sido posible en zabalburu

porque en base a esa planificación no cabía concertar más aulas y lo que se ha hecho es llevarlos al centro público

la formación que pidieron en el modelo lingüístico que pidieron yo realmente

cuando recibí la propuesta la proposición no de ley la pregunta que me hacía a mí mismo era dónde estaba el problema

de un centro concertado a un centro público la distancia el cambio de término municipal

porque la distancia en realidad es la misma que hay entre miñano y armentia por ejemplo a ojo de buen cubero

si el problema es que no se haya concertado un aula más en este caso en modelo a es por la imposibilidad normativa

más fantasmas siendo que la elección de ese modelo lingüístico la tomó el centro

claro en ese sentido usted nos pedía en su punto segundo que concertara el gobierno una

en el centro zabalburu cuando la propia normativa y la planificación existente

ad hoc pues no parece la mejor de las alternativas

en un ámbito como la formación profesional donde la normalización del uso del euskera va con retraso con respecto al resto del sistema educativo seamos capaces no solamente de ofertar un ciclo de grado superior en logística y transporte sino que además

haya grupo para poder hacerlo porque ustedes en este tema le dan mucha importancia a las realidades sociolingüísticas y yo no seré quien

cambian evolucionan se mueven y yo creo que es de congratularnos

de que hoy por hoy en el centro zabalburu por ejemplo por poner un ejemplo en bilbao con la realidad sociolingüística que existe en esta ciudad podamos ofertar y tener un grupo y además darle preferencia independientemente de las cantidades que pueda tener de peticionarios

cada modelo lingüístico

creo que el señor pastor ya lo ha hecho nuestra enmienda

a que en base a la ley cuatro barra dos mil dieciocho de formación profesional del país vasco

de forma que se garantice un dominio adecuado de ambas lenguas oficiales por parte de quienes realicen las actividades formativas extendiendo para ello el modelo bilingüe de euskera y castellano punto segundo el parlamento vasco insta al gobierno vasco

siga atendiendo en la medida en que la haya la demanda existente el modelo a

de lo que dice la exposición de motivos de la ley cuatro barra dos mil dieciocho de formación profesional que ustedes apoyaron y si la memoria no me falla en este aspecto no presentaron ninguna enmienda y el segundo su estructuración está basado en el artículo veintisiete de la misma ley y yo creo que atiende a la voluntad

de no dejar a nadie atrás y atiende a esa voluntad por lo tanto dónde

ve usted el problema además

de educación post obligatoria son adultos no son padres y madres

usted empezando desde la justificación nos habla de que la constitución establece y es cierto el derecho de los padres y madres a decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos y bueno después en ese mismo sentido nos habla de lo que dice la ley de escuela pública vasca

muy bien pero vamos a centrar el debate porque estamos hablando de adultos y adultas estamos hablando de mayores de edad

con lo cual yo creo que es que ese punto primero cae por su propio peso

es que no hemos recibido ninguna propuesta ni ninguna llamada para tratar de acordar nada con lo cual realmente

cuando menos es llamativo por lo tanto yo le animaría a centrar el debate

de padres y madres de hijos e hijas estamos hablando de un ciclo de educación postobligatoria y estamos hablando de adultos y adultas de personas mayores de edad eta

egun on bueno voy a probar cómo es esto de no criticar al gobierno

dago un plan de euskaldunización de la formación profesional que fue muy progresivo que es muy progresivo que está construido como ya se ha explicado con los propios centros

mejora de dicho plan pero ese no es el objetivo de esta iniciativa del partido

para otro momento no respaldamos el primer punto porque

ya se ha dado en el anterior punto pero que si lo damos sin tener en cuenta condicionamientos económicos y otros que condicionan de forma mucho más radical que el que usted está

explicando o proponiendo en la elección de los centros tanto en la enseñanza básica como en las enseñanzas

en la universidad es un debate falso y una polémica falsa en la parte de la educación obligatoria ya

en el anterior punto y bueno es un paso el acuerdo que se ha llegado insuficiente pero es un paso y tendremos que trabajar todos en ese sentido

de euskera y la viceconsejería de formación profesional al analizar que este centro tiene el tope ya de aulas concertadas

de conciertos por tanto se abre y se propone un grupo nuevo en portugalete para atender la demanda que hay en castellano yo no sé la distancia que ha hablado el señor urrutia que hay pero bueno de bilbao a portugalete hay bastante menos que de bilbao a cantabria que es el problema que

comentaba y podría haber centrado su iniciativa más que en un caso concreto en la apertura de más centros públicos o en el desarrollo de una fp en la que

más en un centro concertado de la formación profesional por lo tanto sabía perfectamente que aunque tampoco se ha puesto en contacto conmigo aunque

por esta iniciativa tampoco había una voluntad de acuerdo por lo que parece porque

no se ha puesto en contacto conmigo ni siquiera para preguntar por el sentido

usted proponía abrir un aula concertada más nosotros evidentemente como es conocido no estamos a favor de ese modelo

pero no vamos a permitir que si se puede abrir un aula pública se abre un centro un aula concertada no es el debate de hoy

el gobierno que mantuvimos en la ley de formación profesional pero vuelvo a decir como decía al principio que en este caso concreto pues no hay caso creemos que

toda la gente que quería estudiar en el centro zabalburu está estudiando en el centro zabalburu en euskera y la gente que quería estudiar en castellano está estudiando

en un centro público de calidad como es el centro de
repelega por tanto votaremos que no a la iniciativa del partido popular eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna

creo que sí señora ubera si vamos a estar de acuerdo en que hay que avanzar en que es bueno que los alumnos conozcan el euskera cada vez más

pero hay que reconocer lo que hay que reconocer que eran

el triple de solicitudes no estamos hablando de tres o cuatro más o cinco más o diez más no eran el triple de solicitudes

concertado de calidad de formación profesional el ciclo

por los jóvenes era el triple y es así

y quitar esa posibilidad en ese centro de esa aula es avanzar

avanzar con imposición no supongo y eso no es lo normal

usted y usted habla del modelo b pero por ejemplo en el centro de formación profesional de repelega

b hogeita hamar pues esa es la realidad

independientemente de generar recursos de generar posibilidades

para que se avance en el conocimiento del euskera eso está ahí y esto está así nosotros señor pastor completamente de acuerdo

lógicamente se está haciendo los esfuerzos y nosotros lo seguiremos apoyando pero previa planificación pues claro que sí

pero yo no les he dicho nada claro que en su enmienda desaparecía

no de carácter general planteamiento concreto sobre lo sucedido en este

logística y transporte ni hablaban de la situación generada ni hablaban del propio

si usted veía en algún avance alguna posibilidad o les interesa alguna cosa pues

es un toma y daca pero además en el sentido positivo en muchas veces o sea que si hubiesen tenido algún interés en alguna cosa como el señor martínez zatón me

un planteamiento muy concreto y muy puntual y me dice el señor urrutia

es un planteamiento en relación con esas posibilidades de elección a los alumnos les ayudan los padres los padres están perfectamente involucrados también en estos ciclos de cuando

es un concierto entre ellos también entre esa posibilidad de elección efectivamente y es más es más si son adultos y tienen esa posibilidad de elegir modelo a ellos por sí mismos encima menos caso se les hace a personas

con esa capacidad de elección y que luego ven frustradas esas expectativas no ya a través de la mediación de sus padres o madres sino ellos mismos en su capacidad de elección pues peor todavía me lo pone en cualquier caso y referido a la planificación no se podían concertar más me dice el señor urrutia no se podían concertar más porque la orden impide no señor

el artículo diez de la orden dice exactamente

modificación de oficio de la planificación la modificación de la planificación podrá proponerse de oficio

por orden de la consejera consejero de educación política lingüística y cultura mediante

indicada y modificación indicada es que si no se puede

pero hay el triple el triple de peticiones de modelo a se planifique la viceconsejera o el viceconsejero diga

porque hay el triple de solicitudes y tenemos la capacidad y yo tengo la capacidad a través de la propuesta que me hace la consejera de educación de hacer esta modificación y de implementar esta educación tan sencillo como eso señor urrutia tan sencillo como eso

también porque la orden da esa posibilidad y ese es el

como le decía antes a enmienda de totalidad que ustedes nos presentan pues lógicamente va

siga atendiendo en la medida en que la haya la demanda existente del modelo a es que es lo contrario ustedes han hecho el segundo párrafo lo contrario de lo que ha sucedido

legebiltzar buru andrea señor barrio

a todas las demandas a todas bien es cierto que en el centro no se ha podido bien ya le he dicho por qué pero se ha atendido a todas las demandas y se ha creado un grupo

para atender a todas esas demandas y se lo he dicho

en el primer turno al fin y al cabo usted mismo en su justificación nos habla de lo que dice la ley de escuela pública vasca y es exactamente eso lo que ha hecho el departamento

de elección de los modelos lingüísticos que se pidieron

y ha usado los mecanismos para garantizar esa elección

hablaba usted de que se había avanzado

dónde está la imposición dónde está la imposición señor barrio

si se respeta la libertad de elección de modelo lingüístico

dónde está la imposición dónde está la imposición

es que haya una modificación de la normativa ad hoc solamente porque

padres y madres de un determinado centro hay que cambiar la normativa según el artículo diez que usted refería ad hoc ad hoc cuando resulta que es el centro

el modelo porque es el centro el que lo elige entonces no sé realmente

de dónde viene el reproche y en el mismo sentido que no hemos planteado sobre este centro o sea hay que cambiar órdenes hay que cambiar normativa hay que cambiar planificaciones solamente por un centro

noticia y queja por lo tanto mire

seguimos estimando que aquí todos esos principios de los que usted habla se han cumplido y que con respecto a nuestro segundo punto ninguna pero que ninguna contradicción porque se han atendido todos los casos se han atendido todos los casos

volvemos a traer a esta tribuna un tema que ya ha venido

y pensamos como desde el principio lo dijimos y seguimos diciendo lo mismo esto comienza y termina con diálogo entendimiento acuerdo negociación hasta alcanzar una solución que seguimos pensando que es posible lo primero que queremos defender es que somos fieles defensores de la red pública

para toda la ciudadanía pero entendemos también la importancia de la red concertada y más cuando ponen en marcha diferentes planes o proyectos educativos que favorecen la diversidad tuvimos varias sesiones en la comisión de educación sobre este tema

meses muchos meses sin llegar a ninguna solución real

y a medida que íbamos teniendo las comparecencias podíamos observar que el problema seguía y que la solución no avanzaba en absoluto no sé si iba a peor pero desde luego a mejor nosotros nos reunimos supongo que el resto de grupos políticos también con los representantes de los padres de los sindicatos de la patronal de los centros de iniciativa

y nos encontramos aquí ante este tema de nuevo hace unos meses me sentía con escepticismo ante las posibilidades de acuerdo

desde luego tengo muchísima preocupación por cómo está evolucionando esta situación sobre todo coincido con la señora ubera por los alumnos porque al fin y al cabo son ellos los que pierden los que están pagando el pato de este conflicto pierden las horas lectivas pierden escolarización y están ralentizando

y ellos debieran de ser el eje de todo los alumnos y las alumnas por eso quiero volver a hacer un llamamiento a entendimiento entre las partes porque es la única solución es necesario y conveniente escuchamos a los padres y a las madres de la escuela concertada

y a la patronal de los centros de iniciativa social y si en otros sistemas

con el mismo sistema de concertación de módulos que tienen los centros de iniciativa social

colectivo no entendemos por qué lo que fue posible hacer en las ikastolas no es posible hacerlo en los centros de iniciativa social con problemáticas prácticamente idénticas entre unos y otros allí se pudo en las ikastolas aquí parece que es imposible

y también tuvo algo que ver el departamento de educación en la firma de aquel convenio y este caso entendemos que no puede ser menos y que hemos de llegar entre todos a una solución

teniendo siempre como referencia el papel de los alumnos

o que se resuelva solo con dinero que es otra de las tentaciones

deme usted más dinero y salimos del atasco no pensamos que esa sea

vayan a ese sector menos irán a la escuela pública y eso es con algo con lo que no estamos en absoluto de acuerdo esta situación es un conflicto laboral

y la responsabilidad del departamento de educación es la que es desde luego estamos de acuerdo en que se lleven las actuaciones necesarias dentro de las competencias del departamento de hecho nos consta a todos que el departamento se ha reunido en numerosas ocasiones con unos con otros y con los dos a la vez

porque es cierto que compete a parte de la red educativa y afecta a muchísimas familias vascas es por ello que impulsamos con

hacemos una referencia al departamento de trabajo al que usted hacía mención pero usted sabe perfectamente que el departamento de justicia y de trabajo no puede intervenir en un conflicto salvo que exista solicitud por las partes

y eso no solo no se ha producido sino que cuando yo se lo he planteado se han negado a hacerlo

la intervención del departamento de trabajo quieren resolverlo con la patronal y a través del departamento de educación exclusivamente y yo creo que este es un instrumento que no debiéramos perder la oportunidad

a analizar la actualización de los módulos en el contexto de la ley de presupuestos no con gratificaciones extraordinarias

a que teniendo en cuenta la evolución demográfica impulse un acuerdo de recolocación para mantener el empleo y la calidad porque sin duda vamos a llegar también a ese punto habrá necesidad de buscar recolocación a una parte de los actuales trabajadores de la red concertada en los centros de iniciativa social con toda seguridad por lo tanto ese es nuestro puerto de llegada nosotros no somos ni tenemos la posibilidad ya me gustaría a mí

ese conflicto que está francamente enquistado pero creo que con estas tres propuestas intervención del departamento de trabajo si se lo solicitan las partes intervención del departamento de educación en la medida de sus competencias actualizando los conciertos educativos dentro de los presupuestos y por otra parte

después de la solución definitiva creo que abrimos una puerta de salida para un conflicto que está durando ya demasiado tiempo eskerrik asko

señores y señoras parlamentarias como han dicho los que me anteceden un tema que traemos recurrentemente aquí y

porque se habla siempre de equidad

cuando hablamos de la escuela vasca y si hay algo que no hay en la escuela vasca es

equidad entre la parte de la poblacion que elige la educación concertada y la parte de la poblacion que elige

mientras estemos en campaña cada vez que salga que ustedes defienden la enseñanza pública lo va diciendo siempre

tanto como el señor pastor el grupo popular defiende la escuela pública vasca lo que pasa es que nosotros lo que no hacemos

que libremente elige un colegio concertado

sino de quién desprecia a quién quién deja fuera de protección a quién

tanto a la pública como la concertada vamos a ver este problema que tenemos aquí va a seguir

el departamento de educación no entienda que con la crisis se redujeron muchísimos los módulos no solamente el pago de personal

el de inversiones hasta quedar en unas cantidades mínimas y ahora que parece que por lo menos institucionalmente independientemente de lo que vaya a venir no estamos en una situación de crisis el lehendakari nos hablaba del déficit cero

de volver por lo menos a los niveles pre crisis y he oído aquí en esta tribuna en algún interviniente anterior

dinero hay mogollón entre lo que presupuestamos de menos que luego ingresamos más

que esto es lo que ha sucedido desde el año que yo sepa dos mil diecisiete desde el cierre del ejercicio de dos mil diecisiete nadie me puede decir que no hay dinero

y encima no ejecutamos todo lo que viene en el presupuesto o sea que por favor a mí

tirantez económica en la institución nosotros nunca demandaremos

pero lo que no queremos escuchar aquí es que en este momento concreto hay dificultades económicas

entre las dos redes a ver vamos a repetir los números de siempre la administración dedica a cada alumno de la red pública cerca de nueve mil euros y a cada alumno de la red concertada

el cuarenta y nueve por ciento de la educación recibe el treinta y seis por ciento de los recursos o sea que la educación concertada en realidad es un chollo para el departamento

puede fijar las directrices puede imponer los límites puede inspeccionar

por un cuarenta por ciento menos en la concertada que en la pública nosotros vamos a inclinarnos a votar

la enmienda presentada por el partido socialista y el partido nacionalista vasco excepto en el primer punto

porque es la única que habla de módulos porque aquí no estamos hablando

del sueldo de los profesores y profesoras no no estamos hablando de la financiación completa en los tres módulos en el módulo de los empleados por su puesto

y en el módulo de las infraestructuras de eso estamos hablando y la enmienda que ha presentado el partido nacionalista vasco y el partido socialista

con lo cual vamos a apoyar esa pero lo que no podemos apoyar es el primer punto

que esto es una cuestión de trabajo esto no es una cuestión de trabajo

estamos hablando de centros de iniciativa social los centros concertados no tienen beneficio su balance es cero ingresado gastado cero y si algo sobra

vuelve al departamento entonces qué va a hacer trabajo ahí qué va a hacer

a los funcionarios no trabajo no puede hacer aquí nada porque la educación concertada

de convenio de colaboración un convenio de colaboración que le sale fenomenal

mucho más barato que si tuviera él que asumir toda la educación concertada

lo que no pueden hacer es meter al departamento de trabajo pero es que eso queda tan claro que el sueldo de los profesores

lo paga el departamento o sea el departamento no da el dinero a los colegios para que los colegios paguen a los profesores

que es el departamento el que paga a los profesores entonces qué va a entrar trabajo si entra trabajo será contra el departamento

que por el pago delegado no es el que paga a los trabajadores y esto era

una forma de controlar que verdaderamente esos trabajadores reciben el salario

no tú me vas a hacer a mí un pago delegado tú te apartas y yo pago

pues como metamos al departamento de trabajo vamos a tener un follón porque el departamento de trabajo va a tener que ir contra el departamento de educación que es el que paga a ver esto ya es una locura esto ya es una locura

no de dar un salto hacia delante en todo tipo de gasto estamos hablando de recuperar lo que se perdió

en la crisis sobre todo los módulos que no son salariales entonces vamos a votar la que ha presentado la enmienda la señora

me ha dado permiso para solicitarle presidenta que votemos por puntos y así como vamos a votar a favor

no podemos votar a favor el departamento de trabajo como no quiera llevarle a juicio al departamento de educación que es el que paga
no tiene nada que hacer aquí muchas gracias eskerrik asko

bananduta ditugulako gure ikasleak pública y concertada casi al cincuenta por ciento un sistema que genera

estas que tenemos a debate hoy algunas conocidas como la desigualdad en la asunción de la diversidad que tenemos en la sociedad vasca y otras quizás menos

que trae y puede traer la bajada de la natalidad bestaldetik eta lan gatazkekin lotuta gogoratu behar dugu sektore honetako langileak hamar urte

la principal reivindicación

de este debate que se ha querido centrar por algunas intervinientes en el tema salarial todos y cada uno de los sindicatos problema fundamental es el de la recolocación del personal por el previsible cierre de aulas de todos los colectivos no como ese plan del gobierno que rechazaron los sindicatos porque dejaban fuera a

lehenengo mailan enpleguaren mantentzea da también reivindicaciones sobre el reparto de la carga de trabajo que

zarata mediatikoa estamos sí ante un conflicto laboral pero un conflicto laboral que tiene afecciones

y aunque la solución sea netamente laboral entre patronal y sindicatos y quiero dejar esto claro aquí necesita de una acompañamiento claro de un liderazgo claro por parte del departamento de educación porque tenemos una patronal como casi todas o en este caso más

que no ha sido capaz en diez años de firmar el convenio con su plantilla y especialmente hablo

y que ha querido usar el conflicto para hacer política y para hablar de su negociado de incrementar más y más la financiación de su red queriendo además unir todas la limitaciones a la subida de financiación

dónde queda nos preocupa además que el departamento de educación

como un espectador de parte ante un conflicto que afecta a miles y miles de trabajadores y trabajadoras a miles y miles de alumnos y de alumnas en un

de educación que es quien dirige o quien debiera de dirigir la política de educación en nuestro país

educador pasivo pero también compañero de la patronal como aquel momento en el que acusó

en una entrevista en eitb de tener otros intereses ajenos a los laborales en este conflicto una reflexión similar a la que hacía

casualidades no entendemos que esto sea una manera de generar confianza entre las partes

las de siempre por otra parte para poder gestionar este conflicto ez dakit zuei baina

desberdintasunak ez kudeatzea eta borondate falta izatea lo dije en la comisión yo estaría muy preocupado teniendo

que hace este tipo de gestión de los conflictos y de las relaciones laborales no nos parecen unos valores muy edificantes para la educación por parte de los gestores

patronal los gestores de nuestro sistema educativo en definitiva de la subcontratación de la educación que tendría que

valores que nos parece totalmente ajenos a esa falta de responsabilidad para la negociación demuestran las patronales son valores ajenos a una sociedad avanzada que se basa o que se debería de basar en la negociación y en el acuerdo para avanzar y diría además que son valores bastante alejados de los valores

eskola defiende en sus proyectos educativos allá cada cual

juzgar se han dado pasos pero el incremento salarial aprobado

colectivos ya lo han dicho los sindicatos y el gobierno oídos sordos y esa equiparación salarial entre primero y segundo llega nada más y nada menos que veintiséis años tarde y por nuestra parte creo que lo hemos dicho muchas veces en la comisión que si hay que ayudar

todos y cada uno de los sindicatos hemos estado con casi yo creo que con todos juntos y con algunos por separado pero curiosamente y después del emplazamiento que le hice

a kristau eskola en la comisión porque no nos había querido recibir o no

que se les ha pasado en este momento no hemos tenido la suerte de poder contrastar en una reunión bilateral las preocupaciones que tienen ellos y las que tenemos nosotros lo vuelvo a hacer aquí en la comisión no sirvió lo vuelvo a hacer aquí que si hace falta nosotros estamos dispuestos sabiendo que nuestros modelos son

por tanto señores del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi que gestionan este gobierno vasco si somos un país que tiene dos redes

ustedes de gestionarlo y de que no haya conflictos laborales en dichos sectores

de la mesa de la educación pública los sindicatos antes de verano estuvieron aquí también explicando sus preocupaciones pero creo que es responsabilidad de ustedes principalmente

cuanto antes ayudar a solucionar este conflicto cuanto antes y también solucionar los posibles conflictos que pueda haber y terminar de negociar el acuerdo de la educación

no es necesario recurrir a la huelga cuando hay cauces para resolver los conflictos desde el diálogo y el acuerdo eskerrik asko eskerrik asko berriozabal

con el plan de recolocación sabe perfectamente y no voy a hacer porque no me corresponde digo

en los que se dejan fuera a colectivos que van a ser los principales perjudicados por

para poder hacerlo y

se puso de moda el concepto del principio de realidad lo que pasa es esa realidad es muy poliédrica y tiene distintas visiones y ese principio

concertada que al tener una patronal que es incapaz en diez años de acordar con los sindicatos unas condiciones laborales

yo creo que de algunos grupos se piensan que hacer huelga para miles y miles de trabajadores es como no sé como si fuera algo fácil que no les supone ninguna pérdida de poder adquisitivo ni ninguna pérdida en su vida diaria

no lo hacen gratis entonces esos principios de realidad el principio de realidad que existe del partido nacionalista vasco y el principio de realidad que existe de kristau eskola igual hay que

la devolución de los derechos robados durante tantos años sin renovar el convenio colectivo nada más

de hacerlo me parece muy preocupante que sean los responsables de la educación de miles y miles de niños y niñas en este país porque me parecen valores muy poco edificantes para

y acordar con los trabajadores y las trabajadoras con los profesores y profesoras que son los responsables

que en estos diez años tampoco se haya solucionado este conflicto y les recuerdo que tienen abiertas ya las puertas del conflicto de la educación pública eskerrik asko

que me he confundido de tema de hoja alde egin du jendeak

ha salido alguien me he confundido

el acceso y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo en euskadi ha sido tardío y difícil y aún hoy su presencia es menor en todas las modalidades tanto en lo que se refiere a la práctica más recreativa como a la de carácter competitivo o profesional

en todas las estructuras que conforman el sistema deportivo como ha ocurrido en otros ámbitos las mujeres también en el deporte hemos tenido que ir superando barreras explicitas e implícitas e ideas preconcebidas

sociales y culturales que han generado desigualdad de hecho la desigualdad en el ámbito deportivo comienza con su propia gestación que fue ideado

físicas algunos de estos valores como la competencia la fortaleza física

basadas en la fuerza o en las capacidades motrices la potencia o la resistencia no obstante el deporte también es transmisor de valores

no obstante el deporte también es trasmisor de valores como la cooperación y el trabajo en equipo

que proporciona sin duda resulta positivo que cada vez más mujeres practiquen deporte sin embargo este creciente aumento en la práctica deportiva de las mujeres no significa

su motivación hacia la práctica y su permanencia la satisfacción obtenida los incentivos recibidos y los obstáculos encontrados así como la participación

y para la superación de todas estas desigualdades es fundamental que desde las instituciones abordemos entre otras cuestiones

el cambio de valores el fomento y el reconocimiento del deporte practicado por mujeres la superación de las trabas que impiden

el incremento de la presencia de mujeres en los ámbitos de toma de decisiones la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas públicos de desarrollo del deporte la prohibición de las actividades deportivas discriminatorias

y en general la erradicación de los obstáculos que impiden una igualdad real y efectiva para que los hombres y las mujeres del sector deportivo en euskadi

sean producto de una igualdad real y efectiva y además una de las cuestiones que también es importante es la falta de construcción femeninos a nivel deportivo desde elkarrekin podemos reconocemos que en los últimos años se ha tratado de fomentar y promover el acceso y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo y que se han producido avances para esta incorporación

parlamento por ejemplo y de la mano de mi compañera eukene alcanzamos un acuerdo relativo a eventos deportivos libres de violencia simbólica hacia las mujeres

y a estos acuerdos la presencia de las mujeres en términos generales resulta aún inferior

en la práctica federada y en la profesional de este modo y a pesar de que en los últimos años se ha registrado un incremento de mujeres en el deporte federado en euskadi el número de licencias deportivas correspondientes a hombres es superior en cuarenta y cuatro de las cuarenta y ocho

deportivas todo ello pone de manifiesto que en el deporte federado la presencia de las mujeres sigue siendo ciertamente minoritaria y que además se sigue produciendo una clara segregación horizontal según si son prácticas con mayor

masculina o femenina en la situación actual que nos encontramos hoy en día para nuestro grupo parlamentario tal y como avalan estudios y análisis de diferentes personas expertas en la materia en relación con la brecha

en lo que respecta al deporte en euskadi y admitiendo como hemos

los avances y las mejoras en ciertos ámbitos para erradicar la discriminación hacia las mujeres

hay que reconocer que se dan de una forma discontinua descoordinada y sin el respaldo de una línea de trabajo especifica desarrollada por parte de las instituciones este es la principal conclusión a la que podemos llegar si vemos la evolución de las medidas aplicadas para mejorar la situación de las mujeres vascas en el deporte desde elkarrekin podemos hemos presentado esta iniciativa porque queremos fortalecer las políticas para contribuir a la eliminación de la brecha en el deporte y para conseguir una mayor igualdad entre mujeres y hombres y cuando

nosotras partíamos de la ley cuatro barra dos mil cinco del dieciocho de febrero

donde en el artículo veinte se recoge de forma explícita el deber de las administraciones públicas vascas de incluir criterios de igualdad en sus contratos y subvenciones en la misma línea en el séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres de la comunidad autónoma

establece entre sus objetivos el incremento

cláusulas para la igualdad en su actividad contractual y o subvencional

cláusulas para la igualdad y el incremento del porcentaje de subvenciones convenios y becas

para la igualdad hemos podido comprobar que todavía falta mucho para que este indicador tenga una mínima presencia en clubs deportivos que reciben subvenciones y que en sus acciones fomentan la brecha salarial y la brecha en la redistribución de los tiempos tanto de las instalaciones favoreciendo una práctica deportiva desigual entre niñas y niños es decir

y por ello presentamos esta iniciativa y hemos llegado

enmienda de transacción que hemos firmado con los partidos que apoyan al gobierno y con el grupo popular

es necesario y prioritario para nosotras realizar un análisis profundo de la situación actual existente una fotografía de las circunstancias en las que nos encontramos ahora en lo que respecta a las desigualdades entre hombres y mujeres en el deporte para abordar

específica el acceso y la participación de las mujeres en todos los niveles y en todos los estamentos deportivos un estudio pormenorizado que aborde también los sueldos de las personas entrenadoras por sexo así como el uso de las instalaciones

en todos los ámbitos deportivos incluyendo los clubs que reciban alguna tipo de subvención

y dotar de recursos para que se radique la brecha salarial y se visibilice y se fomente

porque el deporte femenino no necesita eventos puntuales o acciones de un día que quedan en el olvido si bien son importantes lo que de verdad necesita

donde se cuente con las mujeres en los cuadros directivos de los órganos de poder relacionados con el deporte si queremos igualdad tenemos que tener

realizar un cambio que promueva la puesta en marcha de estrategias de igualdad en las federaciones vascas a través de la formación y de campañas de sensibilización que se realicen en colaboración con las diferentes o con la unión de federación

de euskadi realizar también guías que contribuyan a la incorporación plena de las mujeres no únicamente en el ámbito deportivo sino

sector es importante que las mujeres lleguen a esos niveles para poder tener una igualdad efectiva y real además

se incorporen cláusulas y criterios para fomentar la incorporación de las mujeres

la última medida de la iniciativa que hoy presentamos y que entendemos que es imprescindible es la que concierne a los medios de comunicación hoy en día como todas sabemos es el deporte masculino y más concretamente el futbol o el que copa en su mayor parte de la programación deportiva de los medios de comunicación en los medios de comunicación se tiene que hablar de deporte femenino hay que acabar con las diferencias en el reconocimiento social de los logros deportivos protagonizados por mujeres necesitamos como decía antes construir referentes las mujeres no tienen modelos por referentes de mujeres deportistas inundando todos los medios de comunicación como sí pasa

las mujeres deportistas deberían pasar por aulas en los colegios para explicar su práctica deportiva y servir siempre como figura de referencia

existe una tendencia a explicar el abandono deportivo de las mujeres como un fenómeno natural que tiene lugar debido a otras prioridades que establecen las mujeres en sus vidas sin embargo la menor calidad de la oferta deportiva dirigida a las mujeres y la distribución desigual de recursos económicos

son factores que influyen en la falta de motivación para la continuidad de la práctica deportiva de las mujeres en resumen hay que reducir la brecha de género

y en aquellos privados que reciban evidentemente algún tipo de subvención pública la ley cuatro barra dos mil cinco

prohíbe otorgar subvenciones a entidades deportivas que discriminan a las mujeres

a partir de la mencionada ley emplaza a las federaciones deportivas a desarrollar planes de igualdad en sus estructuras y a llevar a cabo actuaciones orientadas a impulsar la participación de las mujeres

que no esté dentro de los planes de promoción del deporte y dentro del marco de las normas de igualdad en euskadi ahora bien el problema es la aplicación de estas normativas que queda en mano de la voluntad de los agentes sociales implicados

el principal problema actual para elkarrekin podemos es la falta

y garantizar su cumplimiento falta una planificación general integral con un calendario

y que establezca plazos para poder dar avances en el cumplimiento de la ley y por ello hemos presentado esta iniciativa porque creemos desde elkarrekin podemos

y alcanzar la igualdad real más allá de planes y de indicadores hay que seguir trabajando para traspasar los papeles y abordar

que creemos que esta iniciativa es tan necesaria para que las mujeres puedan acceder y participar en igualdad en todos los ámbitos de la actividad física y el deporte en euskadi

es cierto que la evolución realizada y la presencia de la mujer

especialmente del siglo veinte ha sido una conquista una conquista

mucho que ver esos avances también se han producido en el ámbito deportivo

características del deporte un sector pues

muy importante pues hacerse un hueco en el ámbito deportivo y sobre todo a nivel profesional para las mujeres pues no es fácil no y en ese sentido bueno pues aplaudimos

pues es un tema obviamente muy amplio y que también requeriría un análisis muy muy exhaustivo del mismo y

la iniciativa que se haya traído a este debate parlamentario nosotros y este grupo cuando tuvo ocasión de analizar la iniciativa

consideramos oportuno es tener la radiografía de la situación

como el instituto de la mujer y quién mejor que decirnos cuál es la situación de la mujer en relación al deporte que emakunde consideramos oportuno plantear una enmienda

de la situación y se realizaran en consecuencia las recomendaciones o las medidas pertinentes en colaboración con los clubs con las federaciones

las instituciones que trabajan en el ámbito deportivo creo que además los grupos en la transacción acordada también

un punto pues importante y así se ha recogido como también se han recogido otros puntos de otros grupos y

hartu behar direla diagnostiko hori egin ondoren por otra parte también se habla de impulsar estrategias

de la mano de las federaciones deportivas también se hace una referencia al ámbito de las ayudas

para que se puedan incorporar también criterios que fomenten la incorporación de las

importante es trabajar en el ámbito de la comunicación en el ámbito de los medios de comunicación así como también

intentar también caminar hacia la igualdad en los ámbitos

que como vemos es una cuestión pendiente pero no solo en el ámbito deportivo sino en muchos ámbitos cuando

escalones en cualquier ámbito y sobre todo vamos a ver los puestos de dirección

ocupados por hombres y eso obviamente tiene que ver con que al final las mujeres

no llegamos hay remover obstáculos y me parece absolutamente pertinente ese párrafo por lo tanto pozik eskerrak eman

la iniciativa que hoy nos trae elkarrekin podemos entiendo que en el fondo y en la filosofía estamos todos de acuerdo incluido la señora etxebarrieta porque desde luego en una amplísima parte de su intervención estoy absolutamente de acuerdo creo que podríamos afirmar sin pretender ofender a nadie que el mundo del deporte es un mundo machista en el que todavía nos queda una larguísima

mediática también un mayor protagonismo en esos medios de comunicación a los que también habría que reclamar que efectivamente se retransmita mucho más de lo que se hace y un mayor reconocimiento a las deportistas en cada una de las disciplinas que realizan pero aún con todo

mucho por hacer y que estamos muy lejos de tener una visión igualitaria en el deporte

emakunde a lo largo sobre todo de los últimos años pero también es cierto que

no podemos inventarnos documentos o inventarnos novedades porque la realidad no cambia al ritmo que todas quisiéramos

pero esa revolución no se puede hacer ni a partir del dos mil quince ni llegando ahora casi al dos mil veinte por tanto cuando se citan determinadas cosas en algunas de las enmiendas transaccionales no es más que reconocer lo que se hecho porque se entendió en un momento determinado que había que hacerlo

en proceso de desarrollo y al que hay que seguir exigiéndole un cumplimiento del mismo

efectivamente ha habido un descenso de un noventa y cinco por ciento de la subvención que se recibía aunque parece que el gobierno planteaba una alternativa a esa carrera y se planteaba que se iba a hacer otra pero efectivamente se ha eliminado una carrera que era tradicional que era una de más antiguas y que efectivamente

siguen siendo palpables las diferencias y a día de hoy es innegable la necesidad de seguir trabajando por una igualdad real y en eso es en lo que creo que debemos empeñarnos

que continuar liderando este tipo de luchas y desde luego espero no encontraros en confrontaciones en lo que tiene que ver con esto una de las demandas formuladas es el fin de la brecha salarial que es lo que planteaba la iniciativa la señora garcía entre hombre y mujeres como reivindicación que cada vez asumen más deportistas cansadas de resignarse a cobrar menos que sus compañeros por lo mismo en premios y patrocinios que como todos sabemos reciben una ínfima parte de la que reciben sus compañeros es importante también facilitar espacios en los medios públicos y es difícil cerrar un porcentaje de cuánto más tiene que subir en este caso la televisión vasca en lo que hace ahora con lo que esperamos que acabemos bueno llegando a ver en nuestros medios de comunicación

una responsabilidad mayor y un derecho a exigir es importante el papel de la administración fundamental el papel de las federaciones el papel de los medios de comunicación que creo que tienen una importancia y un poder mucho más de lo que a veces tenemos las cámaras políticas

muy lejos de esa igualdad real en este pleno en la última legislatura es cuando más se ha debatido de temas de igualdad cuando probablemente la sociedad ha empujado a la política a seguir debatiendo sobre estos temas pero para ser capaces de acordar acciones concretas y en lo que tiene que ver con el deporte creo que todavía estamos muy lejos

equipo femenino alavés de baloncesto el araski y creo

pudo ver la diferencia que hay cuando se presenta un equipo femenino

un equipo masculino en la misma ciudad ni a favor ni en contra ni de uno ni de otros quiero decir me parecen los dos importantes además es un equipo alavés en una provincia en la que el baloncesto siempre ha tenido una afición probablemente mayor que en el fútbol pero incluso

creo que todos debiéramos hacernos una autocrítica de lo que había allí porque

que faltan todavía referentes y yo creo que las canteras tienen claras las referencias y yo creo que por ejemplo ese club

y hay muchas niñas que quieren formar parte de eso porque ven más allá de un grupo de en este caso de un club deportivo de baloncesto bueno

es verdad que podemos hacer muchas cosas y creo que desde la política queda mucho que hacer

la brecha que existe en el tema del deporte a veces hablamos del tema

a veces hablamos de lo que ocurre en la política y termino como he empezado el deporte creo que es un ámbito muy machista en el que todavía queda mucho por hacer pero creo que debiéramos de ocupar también nuestros esfuerzos en intentar desarrollar todas esas herramientas que nos hemos ido dando todas esas guías esos documentos esos compromisos que a veces somos nosotros mismos los que somos capaces de crearlos y nosotros mismos los que somos capaces de tirarlos

ha habido un tiempo suficiente para el desarrollo de los mismos por lo tanto creo que todos tenemos muchos deberes en todo esto y

tenga un mayor protagonismo creo que está no solo en la televisión pública vasca que sí en las federaciones deportivas que sí

en los presupuestos en todo lo que queda por hacer pero creo que todo desde un ámbito mucho más pequeño que es el personal cada una de los partidos políticos con los hechos también se puede seguir avanzando en todo esto y ser capaces de ver de demostrar a la sociedad el compromiso que tenemos todos los días nada más muchas gracias

árbitras técnicas médicas directivas y sobre todo a las deportistas es una realidad

y abarca desde las niñas en el deporte en edad escolar hasta las deportistas de élite

en los casos más extremos atentan contra su integridad física y psicológica a través del acoso y abuso sexual

este último aspecto es un claro indicador de la regresión en igualdad donde destaca la gravedad de la imposición por parte de las federaciones de una vestimenta de competición que las

un servicio especializado de información y atención para casos de acoso

en el ámbito deportivo que pretende dar apoyo a las víctimas a su entorno y a federaciones clubes y asociaciones en relación con la citada problemática impulsado

hemos visto también en este caso que era necesario realizar un nuevo análisis una actualización de ese análisis porque si bien es cierto como ha dicho la señora rojo que del quince aquí no ha existido ninguna revolución

sí que a tiempos a pasos agigantados sí ha habido muchos cambios sobre todo sobre todo

por tanto entendíamos que era necesario ese análisis que recogiera recomendaciones que se consideren oportunas de forma integral para fomentar el deporte femenino y que aborde como decía en euskera pues no solo el acceso y la participación de las mujeres en la práctica del deporte también en los ámbitos de dirección o de plantilla

por eso era necesario seguir trabajando en reducir la brecha de género comunicativa en la emisión de información deportiva en eitb si bien es cierto

de eitb en estos años incrementando las emisiones en los últimos años y yo creo que eso tenemos que poner en valor en los últimos dos años las noticias en relación con el deporte femenino han aumentado considerablemente además toda la información emitida en gaur egun o teleberri se cuelga en la página web

al deporte femenino que se alimenta cada día por tanto eso nos indica que todos los días tenemos noticias del ámbito deportivo femenino

la emisión de programas específicos como oreka o programas como helmuga con contenido deportivo tanto masculino como femenino y en julio de este mismo año se publicaba en la página web de la corporación aragonesa de radio y televisión una noticia bajo este titular

y recogía pues que según un estudio realizado por la forta que es la federación de organismos de radio y televisión autonómicos pues se destaca a etb junto con otras televisiones autonómicas

por tanto poner en valor sí y hay que seguir trabajando efectivamente gaia zabala da beraz eta legez besteko proposamenak hasieratik

pasatuz elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza bertatik se me oye bai bai se me ha oído demasiado

igual mejor así no viendo un poco las intervenciones del resto

que sí mantenemos una misma filosofía y un mismo espíritu en cuanto a ahora

ahora y es evidente que bueno primero agradecer a las representantes

porque a nosotras sí que nos parece que el acuerdo que hemos alcanzado es un paso importante y que en una cuestión como esta donde todos entendemos que hay un diagnóstico parecido existe una desigualdad y además

hay que trabajar y hay que tomar medidas y hay que llegar a acuerdos y eso es lo que nosotras entendemos es evidente que queda mucho trabajo por hacer es evidente que queda mucho trabajo también los medios de comunicación que usted los citaba ahora señora arrizabalaga pero queda muchísimo trabajo

muchísimo que hacer por difundir el deporte femenino en muchos ámbitos nosotras señora etxebarrieta sí que es verdad que entendemos que los diagnósticos y los análisis sí son importantes y cuando nosotras lo poníamos en el primer punto hablábamos de algo pormenorizado que hablara también de las diferencias de sexos en las instalaciones

en las personas que entrenaban es decir que íbamos un poquito más allá y por eso entendíamos la necesidad si bien entendemos que ustedes no la compartan

a la emakumeen bira yo comparto lo que usted ha dicho es una discriminación absoluta es una vergüenza que una prueba después de treinta y dos ediciones la misma o parecida prueba a nivel masculino tenga casi ciento ochenta mil euros

de mujeres eso es una vergüenza eso es una discriminación y nosotras hemos hecho una pregunta nosotras no hemos dejado

la emakumeen bira comprendo y comparto su preocupación

vamos a seguir pidiéndole al gobierno que tome medidas para que situaciones como estas concretas

y ya para terminar bueno si usted quiere ser oihana kortazar yo quiero ser